jartzen dira pero no solo la propia creación de la secretaría es una decisión acertada y que como decía refleja claramente la importancia de la apuesta del lehendakari

también las personas designadas para dirigir estas políticas son una demostración de esa apuesta y una garantía de éxito los tres

y txema urkijo desde orígenes muy diversos con trayectorias distintas cada uno desde su propia experiencia vital aportan aptitudes y actitudes extraordinarias para afrontar este reto

básico desu actuación pública sensibilidad y empatía hacia todas las víctimas sensatez y sensibilidad

respuesta prudente conciliadora y empática da pruebas de todo ello no es cierto y es por ello injusto señora quiroga que no se hayan referido a las víctimas lo han hecho reiteradamente lo han hecho en sede parlamentaria y en los medios de comunicación

de verdad justicia y reparación defendiendo la memoria de las víctimas como referente de garantía de no repetición desde el respeto incluso a las críticas injustas que han recibido el objetivo señorías es la consolidación de la paz en nuestro pueblo y no debemos despistarnos del objetivo

son bienes demasiado valiosos como para que los pongamos en peligro con la sobre exposición del debate público exigen consenso trabar complicidades y además del desarme material necesitamos también desarmar la palabra

esforzado en practicar los nacionalistas vascos hemos abogado por el trabajo discreto

para avanzar en las políticas públicas de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo la ponencia de víctimas fue un buen ejemplo de ello también la legislatura pasada ese mismo proceder nos permitió el acuerdo de la ponencia de paz y convivencia un acuerdo de gran valor porque ha sentado las bases desde las que continuar avanzando ahora unas bases compartidas por una amplia mayoría de este parlamento y a las que este grupo parlamentario desde luego no tiene ninguna intención de renunciar por eso la enmienda que hemos acordado con el grupo socialista hoy quiere comenzar con ese reconocimiento explícito

pero hoy queremos reafirmar los principios entonces acordados

requieren el reconocimiento de la injusticia de la violencia el reconocimiento del daño causado y de la dignidad de las víctimas todas ellas merecedoras del derecho a la verdad la justicia y la no hay duda ninguna

no hay rebaja de exigencias ni intentos de blanqueo son los principios firmados también por ustedes y con los que espero que sigan comprometidos nosotros el partido nacionalista vasco y también el lehendakari y su gobierno señora quiroga lo estamos pero

ensimismados este acuerdo la realidad en este país ha cambiado

es cierto que la amenaza del terrorismo no ha desaparecido definitivamente

no solo exigir su desaparición sino trabajar activamente para conseguirlo pero negar la evidencia enrocarse en la repetición de lo acordado sin ir más allá

más bien lo debilita tanto riesgo señora quiroga tiene la piel de elefante

impidiendo su cicatrización por eso

por parte del gobierno de un renovado plan de paz y convivencia

que deberá presentarse en este periodo de sesiones para poder ser debatido entre todos de manera que concitando el mayor acuerdo resulte plenamente eficaz para sus objetivos un plan que con el objetivo principal de consolidar la paz y la convivencia en euskadi

con relación al pasado al presente y al futuro iraganari dagokionez memoria eta elkartasun prozesu batean aurrera egitea

desarrollo de la ley de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo

donde había un acto organizado que se titulaba qué significa deslegitimar el terrorismo y decía que deslegitimar y leo literalmente lo que se decía en ese acto es que superemos

porque aquí no hay guerra y lo que tenemos que defender

y no de derechos humanos para tratar de diluir lo que es la principal violación de derechos humanos que se produce en el país vasco hori esan zuenean

niega el concepto de paz porque considera que no hay guerra

no es solo sinónimo de guerra y paz no es solo ausencia de violencia

es una situación armónica en la que los distintos se reconocen conviven y se respetan

en la humillación no hay paz en la negación de derechos

cuando se ningunean los sufrimientos ajenos zuk ere lehengo egunean hitz egiten zenuen de

que hay que hablar de ello y no hablar de derechos humanos eta nik uste dut hori dela contradicción in terminis porque sin derechos humanos no hay legitimidad diga lo que diga la ley la limitación de derechos humanos puede ser legal

la legitimidad la da la justicia y no la ley aunque algunas violencias son legales ninguna violencia

es la consecuencia de un fracaso del fracaso de la falta de diálogo del fracaso de la incapacidad para solucionar los conflictos por medio de la palabra y eso es lo que impele a la violencia

cuando somos incapaces de enfrentarnos al por qué nos refugiamos en el cómo de lo que se trata

por qué existen las cosas por qué hay violencia por qué hemos vivido esta situación en este país bortizkeria deslegitimatzeko

la manera de deslegitimar la violencia es ofrecer diálogo porque solo cuando ofrecemos diálogo y ese se niega por la otra parte es cuando puedes plantear que una actuación no es legítima la violencia se deslegitima por sí misma cuando habiendo soluciones opciones para solucionar los problemas hablando no se utiliza esa vía

la señora quiroga al final de su intervención preguntaba al lehendakari

si la política que va a desarrollar su gobierno va a estar al servicio de la construcción

o por el contrario al servicio de la memoria justicia y verdad que merecen las víctimas y la

hau da al servicio de la memoria verdad y justicia que merecen las víctimas ere bai noski erantzuna da bai erakundeek

va más allá de estas señorías y la paz y la convivencia va mas allá de nuestras coaliciones y partidos

y la convivencia pertenece

esta legislatura la legislatura que traiga la paz y la convivencia a este país

para la secretaria de paz y convivencia nik ez dut esango ehuneko ehun ados nagoenik

gracias señora presidenta quisiera hacer algunos comentarios a las intervenciones de los diferentes representantes

en cuanto al tercero es que usted hace una distinción que nos parece que es tanto como decir que la secretaría de paz y convivencia es una especie de verso suelto del gobierno vasco no es que

y pedir la dimisión de los miembros de esa secretaría es tanto como decir que tienen vida propia que hacen sus propias declaraciones no están nombrados por el lehendakari con ese objetivo y con ese fin es decir no son personas que hayan sido buscadas así de una forma espontánea

a una trayectoria que es lo que yo hablaba en mi interpelación a una trayectoria y en una dirección que es la que nos preocupa del gobierno vasco

quien ha decidido quiénes son esas personas ha sido el lehendakari y por tanto pedir que se cambie a esas personas sería quedarnos cortos porque lo que importa este gobierno el que está adoptando una dirección en una materia tan sensible que está perdiendo consensos porque yo no sé

porque eso es lo que estamos viendo pero en cualquier caso es el gobierno vasco el que está eligiendo con quién tiene los consensos y con quién avanza en esta materia eso es lo que queremos poner de manifiesto aquí

señor ares yo entiendo sus esfuerzos por intentar clarificar y

que le preocupa que se traiga a este parlamento iniciativas

ustedes trajeron aquí la iniciativa de volver a reiniciar los trabajos de la ponencia de paz y convivencia

pero quisieron traerlo y quisieron debatirlo antes de buscar el consenso y de evitar la situación que estamos viviendo ahora por tanto si ustedes pueden presentar esas iniciativas déjennos que también nosotros

estas iniciativas porque queremos poner de manifiesto que se están buscando otros consensos distintos a los de la legislatura anterior y eso es lo que

y eso es lo que desde el partido popular estamos intentando evitar que se rompan esos consensos usted hablaba del sociómetro y decía

prácticamente no era un problema el terrorismo afortunadamente pero dígame en qué lugar aparece la situación de los presos de eta entre las prioridades y las preocupaciones de los ciudadanos porque aquí le estamos dedicando

y más que se le va a dedicar en la ponencia y ustedes lo saben porque están hablando de avanzar

hay que avanzar hay que avanzar a qué le llaman avanzar porque nosotros hemos puesto

avanzar en la deslegitimación del terrorismo pero ustedes

no vaya a ser en la dirección porque unen avanzar a lograr la disolución definitiva de eta

si la saben perfectamente por tanto en qué se va a convertir esa ponencia

se va a convertir en poner encima de la mesa las reivindicaciones de bildu y lo sabemos

que se establezcan las reglas del juego y a qué se va a dedicar esa ponencia y qué significa avanzar en estos momentos señorías y eso es lo que estamos pidiendo

una vez más que consideramos un gran avance y de verdad

un acuerdo que por cierto no se ha traído a votación a este pleno eso llama la atención pero ustedes saben por qué es porque entonces tendría la negativa de bildu y entonces pondría de manifiesto

porque no se aceptan esas bases y entonces hacia donde estaríamos avanzando yo les pido que reconsideren esta postura y señora mintegi yo le he seguido su razonamiento es un razonamiento que realmente

a reafirmar en las palabras que yo utilizaba

pero mire según su razonamiento la violencia se utiliza por una falta de diálogo por tanto

han buscado ellas su propio asesinato por falta de diálogo porque no han sido capaces de dialogar ahora entiendo por qué estaba usted

justifican todos esos asesinatos porque el origen de todos esos asesinatos según ustedes está en una falta

es su razonamiento eso es lo que usted nos ha venido a decir aquí y eso es en lo que no queremos que se convierta esta sociedad

en las que derechos humanos para ustedes no signifique lo mismo que para nosotros eso es lo que estamos demandando desde el partido popular

gracias presidenta upyd finalmente votará a favor de la moción planteada por el grupo popular votará también a favor de nuestra propia
enmienda de totalidad obviamente y votaremos en contra de todo lo demás responderé a las señora

la señora mintegi hablaba de situación de armonía

situación de armonía se garantiza respetando la legalidad vigente respetando las instituciones democráticas respetando la democracia respetando los derechos humanos así es como se garantiza una situación de armonía es más

con nuestras propias fuerzas con la voz y con a la palabra proponemos iniciativas tratar de mejorar la vida de la sociedad en eso consiste la democracia lo que pasa que existe una formación política que apoya a una banda terrorista que ha pretendido hacer justo lo contrario acabar con todo eso

lo primero que habría que hacer para garantizar esa situación de armonía es respetar todo esto que le acabo de decir y lo que ustedes deberían hacer es lo que hacemos los demócratas

e incondicional y defender las instituciones democráticas esto es lo que ustedes deberían hacer y no hacen ustedes son los que rompen la armonía ustedes rompen la armonía cuando hablan de presos políticos

al resto de parlamentarios insultan a la sociedad y obviamente rompen esa armonía que ustedes reclaman pero que no respetan

del mismo modo que se rompe la armonía cuando hay una formación política recién creada sin subvenciones conocidas que tiene la capacidad sorprendente de pagar los carísimo abogados de una etarra ustedes o sortu en concreto rompe la armonía porque

sobres pero sobre todo hay que investigar los sobres que se pagan a eta y esa es una labor que no se ha hecho nunca en euskadi y que nosotros reclamamos investigar los sobres que supuestamente pagaba el señor bárcenas

hay que investigar obviamente los sobres recibidos y no declarados por una banda terrorista investiguemos pues también eso

un partido político recién creado sin subvenciones públicas conocidas tenga esa capacidad de pagar los servicios carísimos de abogado para un

habría que investigar habría que investigar todo eso para que efectivamente haya

en este país pero ya digo ustedes son los que rompen la armonía

no respetan las instituciones democráticas que es lo que hacemos todos los demás aquí presentes usted ha venido a preguntarnos claro se dicen tantas cosas por parte de ustedes que ya casi ni nos sorprenden

por qué hemos sufrido violencia la señora mintegi nos preguntaba por qué hemos sufrido violencia

y al hacer esa pregunta la señora mintegi lo que hace es volver a pretender justificar

cómo que si hubo violencia fue por algo sin embargo

usted que decir y lo que todavía no ha hecho y por otro lado y para terminar es curioso dice

yo había entendido a los partidos políticos a la mayoría de los partidos políticos que ya vivíamos en paz puesto que eta ya había anunciado

y efectivamente nos confirma que lo que se pretende hacer

por parte de eh bildu otra vez es pretender chantajear al resto de partidos políticos

según ustedes mientras no asumamos sus postulados

usted a decir lo que ha venido usted a decir cuando ha planteado

que efectivamente algo tendremos que darles a ustedes para que eta se retire

ante ese discurso nos oponemos absolutamente lo denunciamos

y llamamos nuevamente al resto de partidos políticos es decir a los partidos políticos democráticos a caminar juntos para conseguir la derrota definitiva

en eso deberíamos centrarnos en caminar los demócratas juntos para lograr

gracias señora presidenta señorías señora quiroga

de la ponencia de paz y convivencia para continuar los trabajos que todos acordamos y en la ponencia en que todos participamos en la legislatura pasada

es evidente que no solamente hemos procurado buscar diálogo y acuerdos para que participen todos especialmente su grupo sino que hemos tenido la flexibilidad

para intentar buscar la participación de todos y de eso sabe mucho el señor basagoiti

y de no querer buscar el diálogo y el acuerdo porque lo hemos buscado y lo seguiremos buscando

en una política sustentada sobre sólidos valores éticos y democráticos

que tenemos que hacer en esa ponencia y mire usted el problema es que parte de sospechas

y se pone la venda antes que la herida y la ponencia empezará sus trabajos cada grupo que participe en ella podrá exponer

como ya hemos dicho partirá de lo que ya hemos acordado en la legislatura pasada y creo que el mejor camino para defender sus posiciones

y que vayan allí y defiendan sus posiciones con absoluta contundencia y claridad como por cierto

en todo caso hoy mismo la enmienda que vamos a votar después la enmienda transaccional no se le puede acusar de ambigüedad porque dice que queremos avanzar en una política de memoria verdad y justicia dice que el objetivo fundamental es conseguir que

recoge que tenemos que ir a un espacio de encuentro social sobre bases democráticas respeto a las reglas de juego a la pluralidad y la defensa de todos los proyectos políticos democráticos pueden convivir con normalidad se acepta que se siga trabajando para aplicar y desarrollar la ley

y que se siga trabajando también para que desde el consenso

atender y reparar vulneración de otros derechos humanos y estoy convencido porque así se ha expresado también en otras ocasiones que sobre todo esto el gobierno tendrá

de que sobre estas cuestiones procure no solo buscar el consenso previo

escuchar y traer aquí a debate sus propuestas para poder buscar consenso amplio entre todos por eso creo que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para no partir de sospechas sino de realidades en el trabajo que cada uno tenemos que hacer señora mintegi usted decía que no puede haber

no puede haber una verdadera convivencia si no se asienta sobre sólidos valores éticos y democráticos no puede haber una verdadera convivencia si no se asienta sobre el respeto a las reglas del juego por todos respeta las reglas del juego y la legalidad

y yo creo que tiene una oportunidad ahora precisamente para reafirmarse en esos principios

porque ha sido uno de los factores fundamentales de vulneración de derechos humanos y abandone esa pretensión

en un conflicto político en euskadi tenemos muchos conflictos políticos hay discrepancia sobre el marco jurídico político sí pero no consiguió eta arrancarnos con la violencia ninguna imposición de lo que sería su proyecto totalitario

que paguemos precio por su participación política

sus propuestas representan a una parte de la sociedad no a todo el pueblo vasco busquen votos

cámbienlas si no les gustan y defiendan su proyecto político con la palabra y respetando las reglas del juego y la legalidad que les hemos dado porque otra vez ha vuelto hablar

aceptar no se lo podemos aceptar porque es una justificación indecente inmoral del terrorismo y de eta y ustedes

tienen que tener la valentía de reconocer el daño causado por el apoyo y la justificación que le han dado al terrorismo en el pasado tienen que asumir que se equivocaron

cuando defendieron por ejemplo aquello que se llamó socializar el sufrimiento tienen derecho a evolucionar sí

pero tienen la obligación de reconocer los errores de su pasado porque será la única forma de que podamos convivir juntos en el futuro sobre bases sólidas
éticas y democráticas de convivencia paz y libertad eskerrik asko ares jauna

presidente andrea señora quiroga decía usted que parece que el gobierno prefiere pactar con bildu que continuar

incidiendo en los acuerdos alcanzados hasta ahora y yo entiendo los problemas del partido popular

los marcajes a los que se ve sometidos en esta cámara y fuera de ella pero abandonen los prejuicios se lo he dicho

no azucen fantasmas inexistentes para justificar una postura difícil

incorpórense al acuerdo sean valientes para defendiendo sus posturas sin renunciar a ellas en el debate puedan participar y puedan incorporarse a los consensos en los que ya han participado y sobre los que

irrenunciablemente los acuerdos futuros usted preguntaba qué es avanzar y yo

el tercer punto de la misma ahí está definido claramente qué es avanzar avanzar en las políticas de memoria como garantía de no repetición avanzar en el respeto a las víctimas avanzar

normalización política avanzar en la construcción de una sociedad en la que convivamos

el principio básico del respeto a los derechos humanos y usted decía que por qué no se ha traído

está en el primer punto de nuestra enmienda transaccional está en el primer punto de la enmienda transaccional en los principios básicos del acuerdo

y sinceramente si ustedes hubiesen actuado con la valentía que se exige en estos momentos con la sinceridad que exige

usted sabe y yo sé que hubiesen firmado esta enmienda transaccional y todavía

la señora mintegi decía que paz es un estado en el que los distintos se reconocen y se respetan y yo estoy de acuerdo efectivamente

en el reconocimiento y en el respeto pero para eso es necesario señora mintegi mayor valentía reconocer sinceramente y no solo de palabras el daño causado en el debate anterior y no lo voy a volver a repetir pero ese es el camino mayor sinceridad y mayor valentía a la hora de reconocer y respetar y decía también que toda violencia es fruto de un fracaso sí es

la violencia ejercida y sufrida en este país no es solo eso

fruto de la decisión consciente y voluntaria de unos para imponer un proyecto político a otros o a la mayoría a través de la eliminación del adversario político eso es la violencia en este país y para eso es necesario además

bonitas como que la violencia es fruto de un fracaso reconocer que no es solo eso que hubo responsables mientras

pudieran existir problemas para defender proyectos políticos todos hemos tenido

proyectos políticos y sin embargo eso no justifica el uso de la violencia el acudir a la eliminación del adversario para imponer

los derechos humanos son absolutos y universales están por encima de las leyes pues estoy de acuerdo con usted por encima de las leyes positivas de cada estado

sirve para los estados y sirve para los colectivos y para los grupos políticos nosotros siempre hemos estado en la defensa de todos los derechos humanos para todas las personas en todos los momentos y en todas las situaciones a ello a eso es a lo que se refiere las conclusiones de la ponencia de paz y convivencia de la legislatura pasada ese es el referente básico de ese acuerdo

para avanzar en la consolidación de la paz y la normalización política nosotros no pedimos a nadie que renuncie a sus proyectos políticos pero sí a que reconozca los derechos universales el valor de la vida humana es un absoluto ético previo previo a cualquier proyecto político y está por encima de cualquier proyecto político

y lo estaba antes también cuando algunos por determinada táctica o determinada estrategia lo ponían en solfa nosotros para terminar reafirmamos nuestra voluntad de hablar de trabar consensos y de construir acuerdos sobre bases sólidas

me da igual que sean nanoacuerdos como se refería el señor barrio

en este caso tampoco es importante el tamaño por eso yo les adelanto que procuraremos desde el parlamento evitar la sobreexposición de este tema

en el objetivo que creo que todos compartimos que la sociedad nos demanda

ezin da aurpegiratu que nos hubiese gustado que se sumen otros grupos

hay una cosa que no me deja impasible no se puede decir que estuve tan campante

a una víctima no se puede decir en absoluto porque absolutamente todas las víctimas

causa política porque no es un accidente de tráfico no es un infarto no es un cáncer es una tragedia eso es una tragedia

evitables absolutamente evitables porque tienen un origen político y eso depende de la sociedad depende de las personas
depende de los políticos son evitables mesedez

estar tan campante en un acto donde estamos homenajeando a una persona que ha muerto por una causa política sea quien sea no

galdetzen duzu qué es avanzar avanzar es que nuestros hijos no conozcan lo que hemos conocido y lo que estamos conociendo eso es avanzar perdón

avanzar es intentar poner las bases de otra cosa

mesedez avanzar es intentar arreglar hablando eso es avanzar respetarnos escucharnos eso es avanzar

quiroga andrea cuál de ellas la transaccional sí

nola bozkatu nahi duzue puntuka el primero y el cuarto

muchas gracias presidenta la verdad es que cuesta continuar con los debates parlamentarios después de haber escuchado lo que hemos tenido ocasión de escuchar recientemente

en esta cámara que pretende seguir justificando las acciones criminales de eta

cuesta seguir defendiendo la voz y la palabra en esta cámara y seguir adelante en esta
jornada de debate mientras hay un grupo maneiro jauna barkatu

laugarren puntuarekin aurrekoa pasa da insisto que cuesta continuar con los debates

estoy intentando continuar con los debates democráticos en esta cámara pero es ciertamente complicado cuando hay un grupo político que sigue justificando las acciones criminales de eta cuesta mucho continuar

quiero utilizar la voz y la palabra pero cuesta

voy a tratar de continuar mientras los representantes políticos de eta siguen aquí

continuaré por respeto a los parlamentarios democráticos que hay presentes en esta cámara

por ninguna otra cosa el pasado día veintidós de febrero le interpelábamos al señor lehendakari sobre los propósitos de su gobierno respeto al futuro de las delegaciones del gobierno vasco en el exterior

al señor lehendakari le gustaría que fueran embajadas tal como llegó a firmar en el transcurso del debate en la interpelación yo le recordaba

acabó su mandato con delegaciones de la comunidad autónoma abiertas en madrid bruselas chile méxico estados unidos argentina y colombia y que todas ellas suponían cinco punto uno millónes de euros anuales a cargo

y le recordaba que era intención de aquel gobierno abrir nuevas embajadas en reino unido alemania francia y canadá para lo que en el presupuesto de dos mil nueve

y le recordaba que el gobierno del señor lópez llevo a cabo algunos cambios unificó

y mantuvo abiertas las de madrid bruselas chile

sobre perú colombia a la que sumó venezuela y américa central

además aquel gobierno desistió de abrir nuevas sedes además en la estructura de lehendakaritza se mantiene una delegación para la cooperación transfronteriza y una delegación en madrid estamos hablando

que tenemos que seguir pagando los contribuyentes vascos por este asunto el anterior ejecutivo se empeñó en vendernos la idea de que estas embajadas servían solo

la internacionalización y el asentamiento de nuestro tejido industrial y de nuestros productos en países emergentes

fue consecuencia esta decisión de no cerrar estas delegaciones fue consecuencia

que todavía grupos políticos tienen hacia el nacionalismo vasco ya digo que para ayudar acompañar

y su red de oficinas presente en sesenta países que han venido realizando un buen trabajo así el pasado año

de lo que no tenemos datos es de lo que hicieron las delegaciones en el exterior el trabajo para la expansión la internacionalización y el asentamiento de las empresas vascas en el mundo

con las oficinas y consultores de la spri que además son los especialistas en estos temas mucho más que los políticos que se nombran para las delegaciones además el gobierno de españa y el ministro de exteriores han propuesto con buen criterio

se integren dentro de la red con la que cuenta el estado con vistas a alcanzar un mayor grado de ahorro y eficacia que en los tiempos que corren de crisis económica es más importante que nunca sin embargo de aquella interpelación

de upyd sobre este mismo asunto e incluso a una misma enmienda de totalidad planteada por el grupo nacionalista vasco a esta moción

con la que cuenta el estado para alcanzar un mayor grado de ahorro y eficacia sino que pretende en última instancia multiplicarlas y utilizarlas además para avanzar en eso que los nacionalistas llaman nación vasca en el mundo es decir en la consecución en última instancia político nacionalista e insisto con el dinero de todos los vascos o la respuesta del lehendakari urkullu sobre la necesidad de internacionalizar euskadi decía

behintzat hala uste dugu abertzaleak sentitzen dugunok gure burua eta bihotza nuestra petición de cerrar las delegaciones vascas en el extranjero viene a decir lo siguiente utilicen ustedes

internacionalización de nuestras empresas y utilicen ustedes el instituto etxepare

pero no utilicen ustedes ni un solo euro de los ciudadanos vascos para construir una nación vasca en el mundo no utilicen ustedes ni un solo euro de los ciudadanos vascos para vender por el mundo la matraca el separatismo o que somos un estado independiente de españa porque afortunadamente no lo somos

españoles y europeos no utilicen ustedes en definitiva un euro de los ciudadanos vascos para defender por el mundo el proyecto político del nacionalismo al menos que quede claro que en este parlamento hay quien se opone de manera contundente a ese propósito de adoctrinamiento

esto es lo que básicamente propone esta moción pedir al gobierno decir al gobierno exigir al gobierno que no utilice los recursos de los ciudadanos vascos para defender su ideología nacionalista sino que cierre todo aquello que pretenda tal cosa

lo pedimos por lo tanto con doble motivo porque no queremos que se utilice nuestro dinero para defender el proyecto político nacionalista la matraca nacionalista en el exterior y desde el exterior y porque no nos sobra precisamente el dinero sino más bien todo lo contrario este gobierno

que nos saquen de la crisis económica y a impulsar medidas que hagan que cada vez haya menos desempleo y pueda impulsarse la creación de empleo de ahí por lo tanto nuestra moción proponemos instar al gobierno vasco a cerrar las delegaciones de la comunidad autónoma en el exterior ya que sus funciones están suficientemente cubiertas por las embajadas de españa y por las oficinas comerciales

efectivamente ya oímos el otro día la respuesta del lehendakari a la interpelación del señor maneiro y hoy vemos la

a la moción del señor maneiro o sea que no solamente no van a cerrar las delegaciones que están abiertas sino que van a abrir

bastantes más bueno este tema ya lo hemos

hace un año exactamente el pleno del veintinueve del tres del dos mil doce pues ya dejamos claro nuestra posición en relación con las delegaciones vascas en el exterior y ahora

por la falta de recursos pues nosotros consideramos procedente la iniciativa que se presenta

socialista esta intención suya y nuestra de reducir el entramado en el exterior no se llevó a buen puerto pues imagínese usted ahora

iniciativa lamentablemente esta moción pues lo que

con que el parlamento vasco apruebe precisamente lo contrario no sé lo que hará

podemos tener un problema mi grupo está de acuerdo con lo planteado

hemos presentado una enmienda de totalidad porque nosotros entendemos que la delegación vasca en bruselas tiene cometidos distintos cometidos importantes

ya me centro en el concepto de unión europea de unión económica en ese concepto puramente de construcción europea y en ese sentido yo lo veo como una labor de intermediación y una labor de proximidad que desde luego nos interesa a los vascos en ese contexto tan importante de unión europea yo estoy de acuerdo absolutamente de acuerdo y lo hemos compartido ya lo hemos hablado con el

empresarial para nuestra presencia cultural por el mundo y utilizar al instituto cervantes

los consulados y las embajadas de españa y las oficinas comerciales del reino de españa en el mundo no son necesarias las delegaciones vascas en el exterior salvaguardando por nuestra parte de la unión europea

y esta por el concepto superior de la construcción europea a la que me he referido antes pero no son necesarias las delegaciones vascas en el exterior las delegaciones vascas en estados unidos canadá méxico y su oficina en méxico

paraguay y uruguay las de chile y perú o las de colombia venezuela américa central no son necesarias y hay que aprovechar

las estructuras diplomáticas españolas y de la unión europea las embajadas de españa sus consulados

muy potentes en estas zonas del mundo muy potentes y en ese sentido eso es lo que habría que utilizar y eso es lo que

a las comunidades autónomas a incidir a trabajar en ese sentido y por ello yo creo que ese ofrecimiento es importante que es normal

no son necesarias van en el sentido de lo que dice la enmienda de totalidad van para fortalecer nuestra identidad

que se van un poco al margen de las necesidades no son necesarias y tampoco es señor maneiro necesaria y lo comparto con usted la delegación de cooperación

cuestión que perfectamente puede estar integrada en la dirección de asuntos europeos del gobierno vasco de la secretaría general de acción exterior perfectamente

por lo que yo en aras de la brevedad este debate ya se ha producido nosotros compartimos la inquietud que manifiesta la moción del señor maneiro nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad pero en cualquier caso apoyaremos

la moción del señor maneiro y esperemos que esta cosa no se vuelva contra nosotros muchas gracias eskerrik asko

y un nuevo impulso a las relaciones exteriores vascas que en los últimos treinta años

obsesiones partidistas dimos pasos fundamentales en la organización interna del gobierno vasco relacionando directamente la política exterior con las oficinas de la spri

y creando y adscribiendo a la presidencia del gobierno la agencia vasca de cooperación todo ello para buscar la necesaria unidad de acción sobre

avanzar en coordinación con cuantos agentes y personas actúan en el exterior consideramos que la acción exterior debe ser transversal y como decía debe darse en unidad de acción y complementándonos por supuesto con los ámbitos existentes

adostasuna lortzea inportantea dela euskadiko kanpo harremanen oinarriak ezartzeko denon artean la acción exterior del gobierno vasco para los socialistas vascos debe responder fundamentalmente a estos retos el crecimiento económico la generación de empleo y la competitividad de nuestras empresas la proyección de una sociedad

para traer inversiones personas cualificadas y visitantes debe contribuir a mejorar la gobernanza mundial para afrontar adecuadamente los retos globales y también debe contribuir a difundir de sus manifestaciones y creaciones culturales

para ello impulsar las relaciones con los ciudadanos y las ciudadanas vascas que viven en el exterior participando activamente en la unión europea

la internacionalización de nuestras empresas y de nuestra economía

y nuestra lengua vasca cooperando al desarrollo y cooperando con otras regiones en especial con las más próximas y representando y defendiendo los intereses de la comunidad autónoma

corea y turquía para los socialistas vascos el objetivo central de la política empresarial y de la acción exterior debe estar para el apoyo a la internacionalización de la economía y de las empresas vascas es necesario que nuestras empresas añadan

hazkunde perspektiba handiak dituzten eta goraka ari diren lurraldeetan por eso apostamos por continuar la línea de trabajo de la legislatura pasada

y el instituto etxepare para desplegar todo el potencial de la acción exterior de euskadi y todo ello por supuesto

para aprovechar al máximo las energías y las estrategias de todos así mismo para nosotros los socialistas las personas que residen en el exterior las empresas implantadas

la presencia vasca en el exterior es cada vez más relevante y más creciente cada vez hay más personas que viven en más países por eso también creemos que la acción exterior

para todas estas personas que residen fuera mantener una relación directa y una vinculación a partir de vías de colaboración entre ellos y nuestras instituciones o entre ellos y nuestras empresas además estamos convencidos de que estas personas pueden contribuir activamente a proyectar una imagen actual de euskadi como una sociedad dinámica y avanzada de europa

la cultura y el euskera y que también están deseosos de participar en una estrategia de euskadi en el exterior todas estas personas además

un caudal importante con el que colaborar fomentando su relación con los objetivos de la proyección vasca en el exterior por todo ello por todas las razones aquí explicadas no compartimos la propuesta original de desmantelar la red existentes creemos que la acción exterior es una política importante para nuestra economía para nuestro país y creo que deberíamos acordar unos mínimos

importancia así lo plasmamos en nuestra enmienda esa es la posición del grupo socialista y es lo que mantendremos muchas gracias eskerrik asko

diez años después su obsesión por situar al país vasco en el mundo como estado independiente

y la función de expansión e internacionalización de las empresas vascas lo está por la red

bi mila hamabiko uztailean upyd exige a lópez que cierre las embajadas creadas por los nacionalistas gaur ere

el miedo reverencial hacia el nacionalismo vasco del lehendakari

eliminando las sociedades chiringuito y cerrando las embajadas para acabar con la paranoia de que este es un país independiente

hamar puntua supresión de la disposición transitoria cuarta que afecta a navarra oncea supresión de la disposición adicional primera que consagra los derechos históricos

las lenguas no tienen derechos políticos y por ello se suprimirá el artículo tres punto tres de la constitución española artículo peligrosísimo para cualquiera que haya leído la constitución española y que habla de la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de españa

y de la consecuente eliminación del cupo y de la aportación el punto ocho de ese programa habla de la representación internacional expresamente dice que debe ser competencia exclusiva e intransferible del gobierno de españa

viene haciendo el representante de upyd en esta cámara con respecto a los que él llama las embajadas vascas y en el punto treinta y ocho esto ya me llamó la atención

upyd aboga por la supresión de las oficinas comerciales autonómicas en el exterior cosa que visto el planteamiento del texto de la moción que nos presenta resulta bastante contradictorio

porque su función está perfectamente cubierta por un lado por las embajadas españolas y por otro lado por esas oficinas de la spri que han llevado adelante más de quinientos proyectos según sus propias palabras pero visto el programa electoral de upyd no me extrañaría que si este empeño con

mociones o proposiciones no de ley para supresión de las oficinas

duena hala gertatuko balitz la cosa esta les salga en contra eskerrik asko eskerrik asko

en primer lugar si usted reconoce la existencia del gobierno vasco

como así lo reconoció en su momento el propio tribunal constitucional si usted señor maneiro está disconforme con este modelo y prefiere el modelo preconstitucional y preestatutario para las provincias vascongadas

solicite la disolución del gobierno vasco y del parlamento vasco y entregue su acta de parlamentario sería la forma más coherente de actuar contra ese perverso entramado autonómico que según sus palabras dilapida todos los recursos de los y las españolas

nuestro grupo eh bildu quiere que se mantengan las delegaciones del gobierno vasco en el extranjero y que se amplíen según los intereses y necesidades de la población vasca

hasta el día en que haya una embajadora vasca en madrid y una embajadora vasca en parís

queremos que el nombre de euskal herria sea en el extranjero un sinónimo de solidaridad internacionalista un ejemplo democrático para otros países y un referente de luchas populares en la búsqueda de una sociedad más libre y más justa desde luego queremos que el nombre de euskal herria sea todo lo contrario de una marca españa apadrinada por los monstruos de la crisis y del capital como banco santander inditex

sí gracias presidenta bueno en primer lugar tal como decía el señor

se debatió sin éxito la pasada legislatura ya me van conociendo ustedes cómo soy

reitero determinadas iniciativas cuando veo que efectivamente no salen adelante incluso en muchas ocasiones me he quedado solo por defender en aquello en lo que creo no tengo mayor problema en esta ocasión esta iniciativa que recibirá el

no tenemos ningún problema en que no salga porque pensamos que nuestra obligación es volver a pedirlo volver a defender aquello en lo que creemos pienso que nuestra obligación es volver a traer aquí todos los debates que sean

es importante no voy a decir que sea el más importante que tenemos entre manos porque el más importante sin duda es la salida de la crisis y la creación de empleo

que pueden ser reutilizados también para salir de la crisis impulsar la actividad económica en lugar de para

los proyectos nacionalistas por lo tanto no tendremos mayor problema en que no salga

nos preocupa más perder debates en todo caso es lo que creemos y efectivamente aquí hay una mayoría al parecer

momentos posteriores habrá ocasiones en las que este asunto pueda ponerse también encima de la mesa depende para qué

reiteraremos esta petición vamos a ver el señor lópez decía literalmente dijo enuna ocasión no queremos

para justificar viajes políticos sin sentido sino que queremos que trabajen para el país y para nuestras empresas y añadió que la red de delegaciones que nos interesa en este momento es la que tenga carácter económico empresarial

a día de hoy ya sabe para qué van a ser utilizadas estas embajaditas en el extranjero para vender el proyecto político nacionalista y para vendernos la matraca nacionalistas así se ha confirmado

y así se confirma de las palabras de la representante del grupo nacionalistas vascos por lo tanto

para que observe también esa situación tome nota

estas delegaciones no van a ser utilizadas para lo que dijo el señor lópez que iban a ser utilizadas sino que van a ser utilizadas para lo que dijo el señor ibarretxe que debían ser utilizadas y en esas estamos a nosotros en todo caso

un disparate nos parece que estas embajadas estas delegaciones son perfectamente prescindibles no las necesitamos son absolutamente innecesarias y efectivamente la representante del grupo nacionalistas vasco parece que ha estado

se agradece que los parlamentarios presenten o preparen bien sus debates en todo caso yo le aclaro que upyd defiende

porque consideramos que hacen un buen trabajo y tienen una función que cumplir esa es la posición de upyd a día de hoy

y defendemos las funciones del instituto etxepare y defendemos la supresión de todos los artilugios nacionalistas para vender su proyecto político en el mundo la representante nacionalista nos ha dejado claro cuál es su idea

defender los intereses de euskadi defender los intereses de las empresas vascas en el mundo que es correcto y otra cosa es vender fuera de euskadi el proyecto político nacionalista

la verdad es que no merece la pena ni contestar en fin ultranacionalismo ultramontano del siglo pasado

no merece mayor atención sin embargo aunque a ustedes les sorprenda

hay nacionalistas sensatos o al menos hay nacionalistas

por ser más concreto fíjense ustedes lo que decía una nacionalista catalana

rahola decía lo siguiente es respecto a las embajadas de cataluña es una vergüenza mantenerlas abiertas

primero porque se están reduciendo gastos básicos para la asistencia a la gente y es imposible explicar

y suprimimos a los profesores para sordos de las escuelas y segundo porque no responde a ninguna estrategia nacional inteligente sino a la afición a montarnos paridas mentales las habituales paridas mentales del nacionalismo y añadía

que no que lo gasten en montajes de nuevos ricos que solo responden a la megalomanía de políticos caducos en esta ocasión estoy de acuerdo con las palabras de pilar rahola

sobran estas embajadas y desde luego sobran cuando el gobierno vasco nos confirma

que van a ser utilizadas para vendernos la matraca nacionalista mientras se plantean recortes sociales contra la sociedad vasca nada más y gracias

comparto la argumentación que ha realizado el representante de upyd hace un momento en relación con esta cuestión hay que priorizar el gobierno

para empleo para inversiones y no necesitamos el gasto en las delegaciones vascas en el exterior que ya ha quedado bien claro para qué van a servir la enmienda del

son para proyectar nuestra identidad y nuestra marca propia está bien claro que lo que se pretende y lo que se quiere en relación con este tema es que las delegaciones vascas

sirvan de nuevo de soporte de algún previsible plan soberanista que en algún momento determinado

entendemos que va a ser así sabemos que va a ser así y en ese sentido por eso y defendemos lo que defendemos lo que ya no tiene nombre es el discurso que nos hace la representante de eh bildu

antes reclamando en el debate anterior las leyes franquistas

y ahora utilizando el término contrario para tratar de descalificar a un estado de derecho en relación con lo que es su acción exterior ha sido una intervención caricaturesca en relación con la seriedad de lo que estamos hablando pero ya vemos que

precisamente para lo que decía yo al principio para que las delegaciones vascas sean el soporte uno de los soportes de ese
plan soberanista que desde luego están reclamando ustedes y a que alguno igual coge el testigo a lo largo de esta legislatura muchas gracias eskerrik asko

muy brevemente simplemente para apuntar que el otro día cuando compareció la secretaria general de acción exterior ya quedó

en general iba bien orientado y que aquello había sido simplemente un lapsus veo que no se le preguntó por cómo iban a ser los viajes del lehendakari al exterior habló de viajes para

la política en euskadi la cultura vasca cuando se le pidió más precisión sobre si iba a acompañar a empresarios dijo que quizás ocasionalmente podían coincidir eso unido al discurso que

y a la probable unión de los votos de eh bildu a la enmienda presentada por nacionalistas vascos parece claro que la deriva de la política

va a retomar los tiempos de la legislatura anterior es decir de la legislatura número octava y por lo tanto lamentarlo profundamente porque creo que

el papel del lehendakari puede ser muy relevante en ese sentido así lo ha sido en la legislatura pasada así lo han manifestado diferentes sectores económicos

y la unión de acción de todos los agentes en ese campo es importante y es necesaria lamentamos profundamente este cambio de orientación pero bueno está bien saberlo para

o reconocer algo que he sólido pensar en más de una ocasión cuando le he escuchado hacer una afirmación que suele realizar de vez en cuando y es que

convicción que demuestra en lo que cree cuando dice aquello de yo defiendo lo que creo aunque me quede solo lo cual me parece encomiable

aunque se traduzca en una insistencia excesiva y lo que ya no me gusta tanto es la vuelta a esos discursos no sé cuando nos han abandonado

nacionalista yo creo que tanta defensa de eso o más la hay

constitucionalista o defensa de la matraca unionista o defensa de la matraca española y cada cual tiene derecho a mantener sus posiciones pero eso de entramado eso de matraca eso de deriva

conceptos que parece que además causan estado y que rayan la memoria ya está bien están de más todos sabemos de lo que estamos hablando y todos sabemos que no estamos hablando de embajadas todos sabemos que

es necesario posicionarse internacionalmente si se quiere sobrevivir si se quiere sobrevivir económicamente es fundamental todos sabemos algunos lo querremos reconocer más o menos

diciendo políticos ni representantes del partido nacionalista vasco ni de otros partidos lo están diciendo los propios empresarios que están sufriendo la situación que está implicando desde hace ya bastante tiempo en el comercio internacional para nuestras empresas eso que se llama marca país españa

todos sabemos que nuestras delegaciones se dedican a ser el instrumento mediante el cual se

empresariales a los agentes culturales a las universidades a los que hacen investigación a los que sean a todos los agentes vascos en aquellos

en los que están ubicados todos sabemos lo que se pretende con esas delegaciones otra cosa es que para mantener el discurso queramos caricaturizar la historia en cualquier caso enmienda plantea algo tan razonable como que se mantengan

sí gracias presidenta tratamos en esta ocasión de lo que

ente público e i te be nosotros presentamos una moción consecuencia de una interpelación

e i te be reduciendo su estructura a la necesaria para ser un verdadero servicio público para la sociedad vasca y

el respeto a la pluralidad la independencia y la imparcialidad y pedíamos que efectivamente el gobierno y el equipo gestor de e i te be pudieran comparecer en la comisión de control cuanto antes para que pudieran explicar las medidas que están

la estructura del ente finalmente hemos llegado a una enmienda de transacción con el grupo popular grupo al que agradezco la disposición para afirmar esta transaccional transaccional que recoge básicamente los dos asuntos que nosotros consideremos

por un lado instar al gobierno a que presente en el plazo de seis meses un plan efectivamente para redimensionar el grupo e i te be adaptando y racionalizando sus estructuras para afrontar en mejores condiciones los nuevos retos

y por otro lado instamos a la nueva dirección de e i te be puesto que estamos ante una nueva dirección de e i te be a algo que nos parece fundamental especialmente ahora quizás en los tiempos que corren y como consecuencia que ha habido

y el grupo socialistas vascos para elegir una nueva directora general

instar a esa dirección a garantizar los principios de profesionalidad objetividad imparcialidad y respeto al pluralismo político manteniendo también una actitud proactiva en la deslegitimación ética y social del terrorismo lo cierto es que

firmada por el resto de grupos no se habla de redimensionamiento nosotros consideramos que es importante proceder

sino porque e i te be debe adaptarse a los nuevos tiempos no se habla en esa enmienda de transacción de redimensionar y lo que se insta a

rigurosa y estricta de sus recursos solo faltaría que no realizara una gestión rigurosa y estricta de sus recursos por lo demás ya digo que creo que nuestra enmienda recoge

las dos patas que nosotros consideramos indispensables a día de hoy redimensionamiento del ente y defensa de la profesionalidad objetividad imparcialidad al pluralismo político lo cierto es que ha habido recientemente un pacto político entre el grupo socialista y el grupo nacionalistas vascos para elegir

sabemos el nombre pero nadie nos ha explicado para qué se ha elegido a esta persona o a este equipo no sabemos nada del contenido de ese acuerdo desconocemos el contenido del proyecto por lo tanto y bajo ese punto de vista a nosotros lo que nos importa además del nombre lo que nos interesa es saber qué va hacer la nueva dirección de e i te be en el futuro no sabemos nada

que han firmado ese acuerdo también lo saben en todo caso para nosotros es absolutamente fundamental trasladarle a este equipo la idea de que debe

y que debe garantizar los principios de profesionalidad objetividad pluralidad que históricamente conviene recordarlo no se han respetado en e i te be

lo que decía a finales del año dos mil nueve el señor idígoras el director de etb en relación a sus primeros meses de trabajo decía aquello de que

que están impidiendo que podamos llevar acabo el cambio que supuestamente era necesario desde luego nosotros compartíamos la necesidad de llevar acabo ese cambio

se dieron cuenta que era muy complicado porque tal como decía el e i te be estaba tomada por sectores radicales del partido nacionalista vasco y la izquierda

un peligro lo que pueda ocurrir en e i te be sabemos que e i te be durante años fue una especie de utensilio al servicio del nacionalismo y así se denunció por parte de otros partidos apolíticos y tenemos

vuelva a producirse esto a partir de ahora en los últimos tres años y medio tampoco ha habido tanto cambio

e i te be pueda volver a ser utilizada por parte de los nacionalistas para

e i te be en una máquina de hacer ciudadanos nacionalistas por lo tanto creo que es importante que en esas transaccional que hemos firmado

de hacer una llamada a la pluralidad a la profesionalidad a la objetividad que durante tantos años ha faltado en e i te be en fin

la moción que hemos presentado y la enmienda de transacción que hemos firmado con el grupo popular a quien agradezco lógicamente

muchas gracias señora presidenta señorías el grupo popular

el fondo de la propuesta desde el primer momento enmendamos a la totalidad con el propósito de buscar un acuerdo entre los diferentes grupos políticos porque somos conscientes de la necesidad

de adaptar y de por qué no hablar también de redimensionar el ente público e i te be para que pueda como compartimos todos durante la anterior legislatura afrontar de manera más adecuada en mejores condiciones los nuevos retos del sector audiovisual atendiendo también además a esas nuevas realidades

económicas actuales en dos mil diez y en dos mil once tuvimos la ocasión de debatir sobre este asunto

desde esta cámara instamos al entonces gobierno vasco presidido por patxi lópez a hacer ese planteamiento en esa dirección

la radio televisión pública vasca a esa nueva realidad

es verdad que hizo muy poco o por lo menos lo hizo de manera

más allá del necesario ajuste que año tras año los presupuestos

de la casa a la que se le obligaba ajustar en contenidos en parrilla

la menor disponibilidad de recursos pero

en lo que era la cuestión trascendental la estructura del ente público no se afectó en ningún caso a la estructura y en cambio todos los ajustes presupuestarios iban claramente a castigar la capacidad de parrilla de la televisión de los contenidos

afectaba claramente y ha afectado claramente también a las posibilidades de éxito de la propia televisión en el mercado actual desde hace años desde luego hemos reclamado una reflexión sobre este asunto sobre el futuro

e i te be sobre la labor que debe prestar en los próximos años sobre

el cumplimiento de sus objetivos y del mandato que tiene también de esta cámara a lo largo de estos años de las medidas a adoptar

alcanzar y para consolidar una programación de calidad que respete la verdad

político y constituya y contribuya a deslegitimar el terrorismo todo ello era indispensable no hay más que mirar a nuestro alrededor

saber que es urgente racionalizar las estructuras la enorme

alrededor de e i te be atendiendo a los cambios que se están produciendo en el sector las nuevas tecnologías la televisión

la tdt y la multiplicación de los canales de televisión hace que necesariamente

las televisiones públicas las televisiones autonómicas nacionales y

tienen que abordar claramente nuevos retos y tienen que adaptarse rápidamente

y no podemos afrontar la nueva situación con recetas del pasado no podemos afrontar una situación que exige decisiones rápidas con las mismas

que se crearon en los noventa para una televisión vasca que a la vista de las decisiones presupuestarias del gobierno vasco en los últimos años se hace insostenible se generó esa superestructura

también como hemos conocido el gobierno vasco actual presidido por considera también insostenible y por eso ha planteado un

del orden del dieciocho por ciento ese planteamiento de reducción presupuestaria sin afectar a la dimensión de su estructura pensamos que va a perjudicar otra vez otra vez va a perjudicar de manera directa la capacidad de establecer contenidos de calidad que sean competitivos en el mercado de la televisión y va a afectar directamente a la parrilla no se toca la superestructura de la casa y toda la reducción económica

de producción que va directamente a afectar a la parrilla y a la calidad de la programación de la casa por eso

abordar claramente un debate serio que el gobierno tiene que hacer un planteamiento a esta casa de cuál es el modelo porque efectivamente todo eso que está pasando tiene que redefinir el modelo de la televisión que nuestra comunidad

creemos que tenemos que hacerlo rápido porque si no se afectará de manera grave a la calidad

de su programación y desde luego no se puede hablar de calidad y lo hacía el proponente sin hablar de una televisión que tiene que trabajar de manera decidida también por ser una televisión con la que se puede identificar una mayoría de ciudadanos y ciudadanas vascas

con la que todos nos podamos sentir identificados una e i te be que trabaje también en defensa del pluralismo del pluralismo político del pluralismo social

una televisión como se decía y como se dice y hemos querido que conste de manera explicita

una televisión pública vasca que trabaje también con profesionalidad defendiendo su imparcialidad en las informaciones y en los contenidos

activo como se dice también en la enmienda que hemos presentado un agente activo en la deslegitimación del terrorismo creo que desde la televisión pública vasca y como servicio público que es y que debe prestar a la sociedad se debe también trasladar y contribuir y desde luego de manera comprometida con los valores éticos

yo creo que tenemos que conseguir que esta sea una televisión capaz de competir de manera desde luego

que claramente preste un servicio público a esta comunidad en un momento tan importante como el actual tiene que ser una televisión que contribuya

y el respeto del pluralismo político y social en nuestra comunidad y que claramente también apoye esos valores éticos y democráticos que

zaude cuando hace una semana dimos nuestra confianza nuestro voto de confianza

lo hicimos por compromiso con un servicio público instrumento que consideramos fundamental

de la ciudadanía vasca lo hicimos para facilitar el funcionamiento

y del fomento y desarrollo del euskera tomamos aquella decisión

e i te be se contribuya a un adecuado desenvolvimiento de los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad autónoma

de apoyar el nombramiento de la señora iturbe éramos conscientes del difícil reto que asumía y así se lo dijimos desde esta misma tribuna

no es otro que el de afrontar la gestión de un ente que está condicionado por la situación de crisis por la reducción de recursos públicos y por la realidad

de las nuevas tecnologías estos elementos están condicionando desde ya la gestión de este ente público no es baladí en este sentido

hace pocos días al consejo de administración nosotros los socialistas queremos que el futuro de la radio televisión pública vasca se aborde teniendo en cuenta estas circunstancias y que se habiliten las medidas para hacer que el ente tenga un futuro sostenible consideramos que la nueva dirección tiene que abordar esta situación y tiene que elaborar propuestas

con sus aportaciones como servicio público los socialistas en línea con el voto de confianza que dimos a la dirección hace unas semanas

se analice desde parámetros de rigor profesional por ello hemos considerado que aprovechando que el plan estratégico vigente caduca a finales de este ejercicio era una buena oportunidad para que la dirección actual se ponga inmediatamente a la tarea de elaborar un plan estratégico para

dos mil catorce dos mil dieciséis esta es la exigencia que hacemos a la actual dirección pero también consideramos que esta no debe verse condicionada a la hora del análisis y de las decisiones que tenga que tomar

sea nuestra mayor discrepancia con las aportaciones que hacen el grupo popular y el grupo de upyd nosotros queremos que el análisis concienzudo y riguroso de la realidad quien establezca

adoptar las medidas necesarias para que e i te be sea ese servicio público profesional y sostenible que todos queremos y que necesita la sociedad vasca por ello porque creemos que respondía mejor a estos criterios hemos firmado con los grupos

y eh bildu una enmienda transaccional que recoge desde nuestro punto de vista todos estos criterios y que además insta

el uno de enero de dos mil catorce creemos que es importante

creemos que es importante que en este plazo de tiempo

se pasen por el comité de administración y se aprueben todas ellas siempre y repito con la intención de que e i te be siga siendo un ente de servicio público

aurreratzea por cortesía parlamentaria esaten den bezala

presidenta gracias a los portavoces por el tono del debate

hemos hecho una primera aproximación al asunto de e i te be hemos

habrá más en las próximas semanas en los próximos meses y en todo caso nosotros estaremos vigilantes para observar lo que hace la nueva dirección y

poder controlar qué es lo que se va haciendo y qué camino

nueva dirección a nosotros es que ciertamente nos parecía extraño que hayamos elegido o hayan ustedes elegido

pero no sepamos nada más a nosotros eso ciertamente nos llamó la atención por eso hemos pedido su comparecencia por eso votamos que no y por otros motivos por eso hicimos la interpelación y por eso hemos traído aquí esta moción y por eso mañana a la consejera le preguntaremos alguna cosa sobre la materia en concreto qué idea tiene sobre la

con la que actualmente cuenta e i te be a nosotros nos parecía ciertamente extraño que se elija a una nueva dirección y no se explique para qué yo creo que lo normal es antes de poder votar el nombre saber cuál es el proyecto no al revés pero bueno en todo caso ya digo

yo al señor uribe etxebarria tengo que decirle que no recuerdo que él me haya pedido que se pospusiera esta moción igual lo dijo

me pidió que retirase la solicitud de comparecencia de la directora general nosotros retiraremos la solicitud de comparecencia en cuanto ella nos lo pida o ella plantee su propia comparecencia en todo caso ya digo que es importante este asunto

de un ente público con un presupuesto de más de cien millónes de euros son más de cien millónes de euros los que pagamos bastante más

para qué y qué se pretende hacer con ello es un ente donde trabajan

respetamos profundamente pero la realidad es la que es y nosotros pensamos que a día de hoy es necesario este redimensionamiento no solamente por la situación económica en la que nos encontramos que también sino porque creo que la realidad audiovisual exige

a los nuevos tiempos y ya digo y también por la situación de crisis económica pero no solamente por eso estamos hablando de un gobierno que está impulsando o va a impulsar todo tipo de recortes recortes sociales recortes para impulsar la actividad económica por lo tanto hay que

hasta el último euro de nuestros recursos y hay que destinarlo a lo realmente importante en definitiva e i te be tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y debe prestar un servicio público al conjunto de la sociedad obviamente debe

el uso del euskera debe informar entretener a los ciudadanos y debe ser un servicio público profesional objetivo plural e imparcial cosa que no siempre ha sido e i te be y conviene recordarlo de modo que sea un ente al servicio de los ciudadanos y desde luego

que no pretenda convertirse en una especie de utensilio al servicio de la causa

esta es nuestra preocupación a día de hoy a dónde destinamos nuestros recursos económicos y qué se hace con ellos y en concreto también nos preocupa la presente y futura de e i te be ya lo decía hace escasos días el señor surio hay que replantear la estructura de e i te be y reducir el número de gestores

tiene razón y esto habrá que hacerlo antes o después por eso hemos traído este debate a esta cámara nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna

traer este debate hoy a esta cámara porque el gobierno ya ha presentado un proyecto de presupuestos y el consejo ya ha rechazado una propuesta de ajuste presupuestaria para ese ente público

necesariamente tenemos que afrontar un proceso de racionalización de su estructura y de redimensión porque e i te be ha venido sufriendo una serie de ajustes presupuestarios porque estamos hablando de un ente público

que no ha modificado en absoluto su superestructura pero en cuatro años hemos pasado de un presupuesto de una asignación del gobierno de ciento sesenta millónes de euros

y cuando nosotros planteábamos algún tipo de enmienda en relación a los presupuestos cuando se hablaba de

en la aportación del gobierno se nos decía no no no se puede rebajar ni uno millón porque afectaría claramente

resulta que se han ido bajando del orden de diez a quince millónes de euros cada año el gobierno vasco propone una rebaja de dieciocho millónes de euros para el próximo año

en el dos mil nueve creo que tenía una asignación de alrededor de ciento cincuenta millónes de euros y este año va a quedar en ciento cinco millónes con cincuenta millónes menos de euros

que se puede hacer la misma televisión con la misma calidad el mismo nivel de contenidos o nos estaban engañando antes y alguien se estaba quedando con el dinero por el camino se estaban malgastando los recursos públicos u hoy precisamente no se puede hacer

luego si efectivamente todo ese ajuste presupuestario se está dedicando a los contenidos

porque de la superestructura generada no se toca nada alguien nos tendrá que decir

porque esto año tras año claramente va a ir a peor necesariamente traer aquí un debate para pedir que el gobierno el departamento la consejera que hoy está aquí en el plazo de unos meses no sé si tienen que ser cinco seis o nueve pero en el plazo de unos meses necesariamente este gobierno nos tiene que decir cuál es su nuevo planteamiento la nueva definición de la radiotelevisión pública vasca porque este debate está en todas partes

es hacernos trampas a nosotros mismos nosotros tenemos que de manera urgente afrontar los nuevos retos del sector audiovisual también aquí y no se puede seguir

cuál es la e i te be que queremos para los próximos años yo creo que ese es un debate

tenemos que abordar y creo que las responsabilidades del gobierno la de traer aquí un plan que podamos todos compartir hacer aportaciones y poder contribuir por lo menos a que esa radio y televisión pública vasca pueda seguir siendo una televisión

señor oyarzabal y señor maneiro yo lo que les quiero decir es que coincidimos en la necesidad de ese análisis coincidimos en la necesidad de la presentación de ese plan

lo que tenemos que tener claro nosotros los parlamentarios es que no tenemos que cambiar los roles con los que tienen la responsabilidad de gestionar a nosotros efectivamente nos toca dar líneas muy generales dar líneas generales nos toca hacer seguimiento de lo que se hace nos toca incluso si ustedes quieren evaluar no nos toca a nosotros hacer y elaborar la gestión de un ente como es el ente e i te be nosotros por eso hemos pedido y en la enmienda transaccional que hemos firmado con eh bildu y con nacionalistas vascos

perfectamente de que se elabore y se presente y se apruebe antes de finalizar este año un plan estratégico nosotros consideramos que un plan estratégico es una herramienta fundamental de gestión de cualquier entidad de cualquier empresa de cualquier

para que en ese plan estratégico se viertan todas las medidas todas las políticas todas las líneas estratégicas que debe seguir el ente radio televisión vasca

tres años por eso creemos que en eso se cifra nosotros instar a que se elabore pero que sean los gestores que sean los técnicos que sean los profesionales los responsables del desarrollo y de la elaboración de este plan estratégico que desde nuestro punto de vista cumple perfectamente

y señor oyarzabal nos han trasladado aquí creemos que ahí se plasmará toda esas si deben plasmarse porque del análisis de la realidad se desprenderán las consecuencias y no al revés que nosotros estemos condicionando el análisis de la realidad
que no favorecen el análisis riguroso y profesional sino que lo pueden condicionar y nada más muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna

que por cortesía parlamentaria como ustedes saben hace escasamente una semana que ha sido elegida

de ellos incluso el día de su elección y posteriores días

algunos mensajes sin embargo por cortesía parlamentaria como es normal y está previsto no nos parece

pues eso cortés el entrar en este tipo de cuestiones sin haberla escuchado

en las próximas semanas la nueva directora general acompañada de la consejera de cultura comparecerá como es normal en este parlamento en esta cámara y explicará cuál es la política que quiere desarrollar y cuáles son sus planes y a partir de ahí

esaten den bezala y yo una precisión el plan estratégico que se pide no es un plan

no es la primera vez mejor dicho que e i te be dispone de un plan estratégico es la continuación de los que han existido y del que existe en estos momentos y que está en vigor

básicamente de un documento de base más importante como es el contrato programa y en el plan estratégico lo que se hace

las misiones la visión y los valores a partir de los cuales se pretende desarrollar una determinada estrategia con una serie de objetivos
utilizar para ello toda una serie de medios eskerrik asko eskerrik asko

a la vista del clima del debate vivido en el pleno he optado por posponer la constitución

de la cámara para que hagan un esfuerzo

la ponencia se constituirá a la mayor brevedad de tiempo posible ante el nuevo tiempo abierto

de abandono definitivo de las armas la sociedad vasca reclama que entre todos consolidemos y sentemos las bases de la convivencia futura el parlamento es el lugar para el debate y para el encuentro

tenemos que dar respuesta a esa demanda es nuestra obligación gai zerrenda agortuta